por cómo funciona la ley de aportaciones ni cuál es su contenido ni tampoco le he preguntado el acta de la reunión del consejo vasco de finanzas yo le he hecho una interpelación de carácter político sobre un espectáculo que ustedes dieron y que genera confusión

usted dé alguna explicación al respecto se ha refugiado en contar el acta y se ha refugiado en explicar algunos aspectos de la ley de aportaciones pero eso en nada da respuesta a lo que yo le he planteado aquí y como tiene un turno de réplica espero que en ese turno de réplica conteste a algunas de las cosas que le he planteado vamos a ver

en el que en el conjunto de la reunión en una reunión de dos actos de un acto

parte donde se da cuentas públicas de lo que ha pasado en aquella reunión hay las siguientes expresiones

de que el producto interior bruto está mal calculado por el eustat esto lo hace un diputado general y usted tiene que salir a defenderlo y además afirma que es un acto injusto

a los propios trabajadores que confeccionan esos datos esto es algo que ustedes han protagonizado que a nosotros nos lo han arrojado a la cara nos lo han servido a través de los medios de comunicación

sobre por qué ocurren estas cosas que a su vez generan una confusión

cómo se confeccionan los recursos para hacer las políticas públicas

de responsables institucionales sinceros y responsables o es una reunión de personas irresponsables

porque ustedes pueden hacer todo por unanimidad pero si cuando salen de esa reunión

como la del diputado general de álava que dice que no puede recaudar lo que se le pide por lo tanto unánime que se ha hecho es un acto fallido que es voluntarioso pero que no se va a ejecutar porque no pueden recaudar lo que se han comprometido a recaudar

otro diputado general que la normativa actual impide recaudar lo que reclama el modelo

que lo que se contiene en esa recaudación en esa previsión

cuando termine el año si además dice alguien que este reparto desvirtúa la ley que la ley es mala y que la ley no sirve si además en un consejo vasco de finanzas anterior a ustedes les plantean que hay que hacer una nueva ley de aportaciones se plantea que se van a hacer unas comisiones

se vuelve a plantear el asunto y se vuelve a dar la misma contestación pasan los meses y no se hace nada

si esto cree que los demás debemos de recepcionarlo

es imposible que sea así entonces yo quiero que usted dé respuesta a este tipo de cosas a mí la sensación que me queda

el resquemor que me queda es que lo que ustedes han definido por unanimidad es mentira

por unanimidad y estamos hablando de los recursos públicos para hacer las políticas públicas para atender las necesidades de crisis de empleo de políticas sociales de políticas públicas para dotar a la sanidad la educación y a todo lo que tiene que hacer este parlamento de recursos

los que se han puesto de acuerdo por unanimidad que no van a poder llegar a esas previsiones

de los representantes institucionales de respuesta a eso y no me cuente cuentos ni como funciona la ley de aportaciones ni si lo hicieron todo por unanimidad lo que hicieron por unanimidad
fue un espectáculo bochornos porque participaron todos eskerrik asko prieto jauna

intelecto suficiente para entender lo que he explicado y no me cabe la menor duda de que usted lo ha entendido perfectamente lo que pasa es que usted está también en otro debate político

en la que tiene usted la doble la doble responsabilidad que tiene usted la doble secretario general

socialista y secretario general del pse de álava entonces yo creo que hay un componente también en su intervención

en relación a esa cuestión yo creo que las responsabilidades cada uno las tiene en su ámbito de actuación entonces uno puede ser diputado general y poder mantener unas opiniones políticas y yo creo que en fin unas opiniones políticas que ejerce un

las ejerce con la responsabilidad que él tiene él tiene la responsabilidad que eso luego origina en las declaraciones

yo lo dije allí públicamente que creo que fue inoportuno del diputado general de álava

para el funcionamiento del país y es que la estadística oficial del país como que funcionara mal

no puedo aceptar porque no está sujeta a criterios de organización de la cadena de mando sino que tiene su propia autonomía y se funciona en estadística oficial

supone que si de eso no tuviera credibilidad no se hubieran aprobado los coeficientes de aportación para el año dos mil catorce por unanimidad

pues sencillamente como se han aprobado durante los últimos treinta y tres años en base al criterio de la renta o del producto interior bruto de cada territorio y de forma inversamente proporcional al esfuerzo fiscal que cada territorio hace con la medida del esfuerzo fiscal del conjunto de la comunidad autónoma que qué engloba pues la capacidad recaudatoria suscitando en una serie de indicadores eso está perfectamente estipulado

planteamientos políticos con los cuales se juegue en otro tipo de batallas políticas en las que yo no voy a entrar en batallas o

y que se juegue con ese tipo de afirmaciones

sobre esa cuestión quedó la materia bien clara y reflejo de ello le reitero

tendrá que pedir usted cuenta o la representación de su partido al diputado general que entiende que todo el sistema institucional

puesto en tela de juicio porque si pusiéramos en tela de juicio nuestro sistema institucional en cuanto a la aportación de los territorios

erróneamente y que por lo tanto todo el sistema institucional queda afectado por eso y los juegos financieros

es un tema de una gran trascendencia por lo tanto yo creo que hay que ser muy prudente en esas cuestiones nosotros aportamos al estado en base a la renta

y los vascos aportan en función a la renta

en materia de sanidad educación política social ertzaintza justicia etcétera

dotados si se quiere mantener un debate sobre el cambio de criterios se puede mantener pero hay que tener yo creo que un sustento un basamento y un

sobre tal cuestión el gobierno está dispuesto ha debatir todas esas cuestiones y le afirmo lo siguiente creo que en esta materia

toda regulación tiene que sustentarse en una serie de principios primer lugar

jugamos con el riesgo unilateral respecto al estado y el riesgo compartido entre las cuatros instituciones

y el conjunto de los ayuntamientos del país en función del esfuerzo fiscal que hagamos segundo lugar suficiencia financiera un sistema que pueda dar los medios para desarrollar las grandes políticas necesarias

de manera que esa neutralidad financiera con los diferentes mecanismos que tenemos bien con el ajuste interterritorial que tenemos en la imposición indirecta y bien con el fondo general de ajuste que juega como cierre da ese mecanismo

en virtud del cual todos los niveles institucionales deben tener una suficiencia de la vinculación de la suficiencia con el de la competencia

en dos tipos de coeficientes uno sustentamos la competencia que es el vertical y el resto que hace una combinación y un ensamblaje de la neutralidad de la solidaridad
y del riesgo compartido con esa finalidad y ese planteamiento es con el que nosotros vamos a abordar eskerrik asko gatxagaetxebarria jauna amaitu da denbora

gracias presidenta señora consejera el día treinta de octubre

realizó unas declaraciones en el marco del primer congreso de seguridad privada de euskadi en las que señalo refiriéndose

lo siguiente a mi no me importa que traigan las armas o no porque al final es entregar un objeto es decir el director

afirma esto al director de la ertzaintza no le importa que eta mantenga un arsenal

no le importa le parece poco importante el desarme de eta afirmó evidentemente otras cosas

también afirmó que a pesar de la reestructuración que se va a acometer en la policía vasca por la que se suprime la división antiterrorista

anuncie su fin menos mal pero en todo caso yo no creo que

deba seguir velando hasta que la banda anuncie

exactamente si no que más bien la ertzaintza lo que tiene que hacer es obligar a eta a disolverse

ni siquiera tiene que esperar a que eta entregue las armas

y a nosotros nos llena de preocupación ciertamente que el director de la ertzaintza diga este tipo de cosas y por eso le preguntamos a usted

que le parecen estas declaraciones realizados por el director

señor maneiro a mi no me importa

porque al final es entregar un objeto lo que me importa es que eta dé el paso que desmantele sus estructuras y su organización esta es la frase

el pasado treinta de octubre en el contexto de su intervención en el primer congreso de seguridad privada de euskadi y este es el mensaje que quiso trasladar a la sociedad

en base a un extracto sesgado de un titular de prensa hable

el desarme de eta yo creo que va más allá de la relativilización y ronda

tan complicado es que los representantes políticos y los miembros del gobierno y el propio gobierno hablen con suficiente claridad para que no tengamos que venir aquí a

lo que he dicho yo que dijo y dijo efectivamente que a mí no me importa que traigan las armas o no esto es lo que dijo y añadió otras cosas efectivamente

entregue o no las armas tiene que quitárselas y no tiene que relativizar

permanentemente me sorprende por qué este gobierno hace

a quién pretende pelotear qué es lo que busca es el director de la policía vasca no es un observador internacional ajeno a lo que ha ocurrido en euskadi

de la ciudadanía vasca todos los medios necesarios para arrebatar a eta sus armas quitárselas y derrotarla esto es lo que tiene que decir no creo que sea tan complicado

o le importa poco o no es realmente lo importante los representantes políticos tienen que hablar claro para que luego no tengamos que venir aquí a pedir

no tiene que esperar tampoco el desmantelamiento de eta

tiene que ser activa para provocar el desmantelamiento tiene que desmantelar a eta eso es lo que tiene que hacer arrebatarle las armas no esperar sentado

en fin señora consejera el partido nacionalista vasco tiene el pasado que tiene en relación a la lucha contra eta una lucha muy limitada

y por eso estamos ciertamente preocupados y por eso le exigimos que no bajen la guardia porque conocemos el pasado y sabemos lo que el pnv ha hecho y no ha hecho
para lograr la derrota de eta eskerrik asko

señor maneiro el pnv tiene el pasado que tiene muy orgullosos estamos de tener el pasado que tenemos no sé si todos pueden decir lo mismo y la ertzaintza tiene el pasado que tiene de haber luchado y de seguir luchando contra eta

insisto además descontextualizar las declaraciones también es una manera de relativizar estas materias de las que estamos hablando y esta materia el final de eta señor maneiro es una cuestión que

ni el departamento relativizarán nunca vuelvo a citar textualmente lo que dijo el señor

a mí no me importa que traigan las armas o no porque al final es entregar un objeto lo que me importa es que eta dé el paso que desmantele sus estructuras y su organización

aunque no estemos en tiempos favorables y los aires parezcan prometedores hay que seguir trabajando hasta que definitivamente la banda organizada anuncie que se desmantela

y usted no está de acuerdo con esto señor maneiro prefiere usted que eta entregue las armas y no se desmantele eskerrik asko

eskerrik asko berriro presidente andrea bien efectivamente los tres últimos accidentes que han tenido lugar entre llodio y

los accidentes están siendo analizados exhaustivamente como no puede ser de otra manera por los propios técnicos de la dirección de tráfico del gobierno vasco

que es quien levanta los atestados usted ha señalado estamos a la espera de la reunión que se va a celebrar la próxima semana el martes concretamente con la diputación foral de álava

analizar cuáles son las causas paratratar de establecer

las posibles medidas correctoras que pudiera establecerse qué criterios los criterios los que nos basamos siempre

triangulo de seguridad esto es analizar la incidencia de vehículo la incidencia

del ambiente que ha podido darse

carretera tipo de condiciones climatológicas y también el factor humano en base a esos tres criterios analizaremos

difícil debatir sobre un tema como este es difícil porque estamos hablando de una situación reiterada tremendamente sensible y que además a afectado

pero también creemos que no por eso podemos eludir responsabilidades tampoco estoy diciendo que lo esté haciendo pero el departamento es una parte

daude ustedes cuentan ahora mismo con un plan estratégico de seguridad vial dos mil diez dos mil catorce y este debería de servir para reducir el número de accidentes el número de víctimas el número de fallecidos y fallecidas pero parece que

no está siendo así este plan no está resultando tan eficaz como debería por lo tanto

y seguramente si ustedes las contemplan a parte de estudiar este caso puntualmente

hay dos radares fijos y uno de ellos lleva calcinado y sin

ahí creo que también ustedes tienen parte

para debatir en otras instituciones a través de emociones y a través de interpelaciones

por la disposición de otras instituciones para ponerse de acuerdo y para de una vez por todas

para que esto no se vuelva a repetir besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco

con el titular de la carretera la diputación foral de álava en cualquier caso los factores de accidentalidad de una carretera o de un tramo de carretera como es el caso se analizan siempre periódicamente que existan circunstancia lamentable como ha ocurrido

de hecho cada mes o bien cada dos meses dependiendo con qué institución hay reuniones periódicas con las diputaciones forales

autopistas para analizar esa siniestrabilidad y como en este caso cuando se dan circunstancias específicas como es el caso de estos accidentes se dan o se realizan estas

en cualquier caso mire el borrador sobre evaluación de la accidentalidad que manejan los técnicos los analistas de la dirección de tráfico arroja dos datos que en principio

al hecho de que haya una víctima un fallecido siempre en un accidente como decía

importantes que además nos debieran servir para por lo menos no

la accidentabilidad se ha reducido prácticamente a la mitad y concretamente

ha sido esa reducción mayor que en el resto de las carreteras de la comunidad autónoma y de álava insisto sin restar importancia

con fallecidos pero como le decía antes el próximo martes se analizará con la propia diputación foral de álava

no hay una única causa para llegar a esas conclusiones técnicas y como le he dicho en función de las competencias que tenemos
cada una de las administraciones adopta las medidas correspondientes eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea

usted lo ha dicho en la fase de instrucción del procedimiento penal del caso cabacas la jueza ha llamado a declarar

y esto es un paso más dentro del proceso penal

la investigación judicial sigue su curso es ahí donde se deben aclarar los hechos y establecer las imputaciones que considere oportunas para poder establecer al final del proceso responsabilidades penales si es que las hubiera pero hoy una vez más se nos inquiere

políticas las cuestiones penales se resuelven aplicando la justicia a través de los procesos penales y las responsabilidades políticas solamente se dirimen en el ámbito político por tanto no voy a insistir una vez más yo creo que queda claro en algo que considero determinante

que complete la labor investigadora que aclare y que establezca las responsabilidades que se deriven y las responsabilidades políticas que se diriman en el ámbito político

yo no pretendo valorar el ámbito penal creo que a nosotros nos corresponde actuar en el disciplinario en lo político supongo

una serie de protocolos para dichas actuaciones que fijan normas básicas de actuación utilización de ciertas armas de cierto material supongo también y digo supongo porque no se nos permite revisar que también existen una serie de registros posteriores a operativos policiales entonces la pregunta

se han cumplido dichos registros sí o no esa es la pregunta si se cumplieron hay una responsabilidad disciplinaria si no se cumplieron una responsabilidad política en cuanto tendríamos unos protocolos

y eso nos parece grave o también

que son conscientes que saltarse protocolos no conlleva ninguna consecuencia alguna en todo caso estamos hablando de responsabilidades políticas

la pregunta le voy a hacer otra cómo valora que entre los cuatro ertzainas no esté entrar en el callejón con todo lo que tenemos cómo lo valora por otra parte según información aparecida en prensa y que no ha sido desmentida por ustedes se nos informa que jorge aldekoa será el nuevo jefe de la ertzaintza puesto de máximo rango en la policía vasca

qué grado de vinculación ha tenido aldekoa en la cadena de mando en el operativo que acaba con la vida de iñigo cabacas es el superior inmediato

con responsabilidades penales responsabilidades penales que le corresponde a la jueza en este caso que lleva el caso concreto es crear confusión y ustedes insisten

el departamento sigue colaborando con la justicia en todo aquello que se le está requiriendo ante estas situaciones que solamente buscan

en torno al proceso judicial se tomó responsablemente

a seis agentes de las funciones operativas desde el departamento lo he dicho lo repito y no tenga ninguna duda que seguiremos actuando con responsabilidad

repito las responsabilidades políticas se dirimen en el ámbito político en el ámbito de las propuestas políticas en su discusión en su acuerdo

entremezclar responsabilidades políticas con responsabilidades penales

por qué quieren crear ustedes tanta confusión en torno a este tema le voy a insistir una vez más en lo que he dicho y he repetido por activa y por pasiva

que complete su labor investigadora que aclare y el departamento como lo he dicho repetidas veces desde luego asumirá acatará cumplirá con lo que la justicia

presidenta señor consejero el gobierno vasco ha redactado el borrador del segundo plan de normalización del uso del euskera

y ya ha comenzado a ser presentado a algunos agentes sociales en ese documento se incluyen medidas como la creación de registros tanto de pacientes como de profesionales del servicio vasco de salud

según se recoge en el borrador en concreto en su página dieciocho las organizaciones de servicios irán registrando progresivamente la preferencia lingüística de los usuarios y se detalla que en la incorporación de nuevos pacientes siempre deberá quedar registrado el idioma de preferencia

se dice estará dispuesto en un lugar visible de la pantalla principal que contiene la información personal de cada paciente no estamos hablando por lo tanto de algo voluntario

nueva imposición los trabajadores si son euskaldunes irán identificados físicamente y podrán registrar su idioma de preferencia en el portal del empleado se prevé premiar el uso del euskera en las relaciones internas y se incentivará a los directivos que logren avances

aportando más medios económicos a través de los contratos programa

entre las muchas propuestas del borrador que no pretende normalizar el uso del euskera en osakidetza sino que el euskera sea la que poco a poco se convierta en la dominante

y con los pacientes y proveedores y ese camino no se desarrolla vía convencimiento no se desarrolla naturalmente de manera natural

de los empleados del ente se hace por imposición imposición obsesiva con medidas coercitivas que llevan acompañados incluso incentivos económicos sin disimulo se pretende dejar

que el euskera debe ser la lengua principal y prioritaria de comunicación siempre que sea posible y se encarga a los directivos que actúen como comisarios lingüísticos a la hora de conseguir el mayor número posible de unidades euskaldunes

el mayor número de reuniones incluso internas en euskera y un largo etcétera

este cúmulo de imposiciones a terceros a empresas privadas

y a las asociaciones de enfermos a donantes y a facultades de medicina y enfermería de la upv todas estas medidas representan en nuestra opinión vuelta de tuerca para tratar de imponer por la fuerza la euskaldunización de la sanidad vasca caiga quien caiga es una nueva imposición

las puntuaciones desproporcionadas y abusivas en la valoración de la lengua vasca del euskera en la sucesivas ope

o la perfilación de todas las plazas más allá que el conocimiento del euskera sea necesario

el puesto de trabajo a ustedes señores nacionalistas todo les parece poco siempre se inventan alguna nueva medida más de imposición

llamada normalización lingüística del conjunto de la sociedad vasca estamos por tanto ante una nueva vuelta de tuerca que pretende dar continuidad

obsesiva pretensión de los talibanes lingüísticos de conseguir la transformación

de toda la sociedad y en ese camino y en el logro de ese objetivo la sanidad es un eslabón más el gobierno en marcha para la transformación lingüística y artificial y forzada del conjunto de la sociedad

el gobierno nacionalista del pnv en marcha para la transformación lingüística y artificial y forzada del conjunto de la sociedad

totalitarios para clasificar a la población o directamente segregarla por su raza o sus ideas políticas o sus creencias religiosas

prefieran expresarse en breve y si nadie lo remedia no habrá ningún trabajador que se atreva a decir

porque será condenado al ostracismo los directivos se encargarán de ello entre otras cosas porque hasta estarán en juego

económicos de su organización es la policía lingüística al servicio de las obsesiones del nacionalismo vasco ciertamente el euskera como suele decirse es de todos y especialmente de quienes lo hablan en todo caso las políticas de imposición lingüística son patrimonio del nacionalismo vasco el catedrático de derecho constitucional de la upv señor

decía hace unos días en un medio de comunicación que los registros lingüísticos tienen serios problemas de constitucionalidad

en varios países europeos pero que se ha desistido de ello por las cautelas y reticencias que genera registrar datos vinculados a la identidad

aquí me temo que no serán tan prudentes como en otros países europeos y en vez de retirarlo

con la complicidad de los más talibanes del lugar quizás modificado a peor

asociaciones institutos consorcios y asimilados que cada día presionan y presionan más para que se imponga en todos los ámbitos de la sociedad en todo caso nosotros lo seguiremos denunciando solos o acompañados pero seguiremos denunciándolo

para conocer cuáles son las intenciones de su departamento al introducir este tipo de medidas en el próximo plan y los límites que se plantea respetar

si es que se plantea respetar algún límite gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak

que a la hora de preparar esta interpelación haya usted leído de verdad

y no me interpele por lo que le hayan contado terceros

en algún medio de comunicación que ha nombrado usted si no fuera así

que se lo facilitare gustosamente debo decirle que he sentido verdadera lástima

comprender ni que lo piense supongo que cada uno tiene su publico

la sensación que tuve al leer la iniciativa y me ha dicho usted textualmente

para tratar de imponer por la fuerza la euskaldunización de la sanidad nueva imposición talibanes

que recuerdan mucho a otras adoptadas y me ha dicho usted

para segregar a la población señor maneiro seamos serios y voy a decir serios por no utilizar otros términos menos amables a usted le parecemos nosotros un gobierno totalitario me dice en serio que cree que pretendemos segregar a alguien ya me gustaría que en segundo turno me explique usted las vueltas de tuerca esas que queremos dar

pero me he debido perder algo o usted o yo hablamos de dos osakidetzas o dos servicios vascos de salud completamente diferentes

dira creame yo estoy dispuesto a dialogar con usted y con el resto de los grupos

para intercambiar opiniones sobre esta cuestión o sobre cualquier otra que le preocupe y cuantas veces sea necesario en el parlamento o en otro foro pero por favor

vamos a hacerlo con responsabilidad vamos a hacerlo con respeto vamos a intentar no ofendernos ni ofender a nadie ni tampoco

estamos hoy aquí en el parlamento y esto es una institución que es fiel reflejo popular de los vascos y las vascas

libremente y se puede expresar aquí en euskera o en castellano como usted elija o necesite bueno pues esto tan aparentemente sencillo que estamos haciendo usted y yo aquí hoy no lo pueden hacer los ciudadanos en osakidetza seguramente no lo pueden hacer aquí cerca

seguramente en el del casco viejo de vitoria y es posible que no lo puedan hacer

aunque sea por un proceso habitual como pueda ser una consulta en atención primaria seguramente o el administrativo

o la medico o medica uno o más de uno no podrán realizar completamente su actividad íntegramente en euskera

los ciudadanos tienen problemas para poder utilizar un idioma oficial señor maneiro un idioma oficial utilizar el euskera en euskadi

osakidetza es una institución pública esta financiada

y sobra que se lo diga porque lo conoce perfectamente no tiene

dónde le parece a usted que está el problema en el euskera en los ciudadanos euskaldunes mire voy a tratar de dejar al margen todo lo que recientemente

sobre el borrador del segundo plan de euskera en osakidetza y voy a tratar de ceñirme a lo que creo me debiera haber planteado en la interpelación

en dos preocupaciones las intenciones y los límites las intenciones de este departamento están recogidas en el plan en las medidas del plan son abundantes

adecuadas y oportunas vienen exclusivamente a favorecer la normalización

esa misma normalización que desde tiempo atrás se viene ya impulsando

cuál es la intención del departamento al introducir estas medidas respeto a los derechos lingüísticos mejora de la calidad del servicio y el principio de progresividad

esto que le voy a decir pero a veces a uno le da la sensación de que no lo es ya que se olvida con frecuencia usted sabe tan bien como yo hay dos lenguas oficiales y que la legislación reconoce unos derechos lingüísticos a los ciudadanos y ciudadanas también conoce que con objeto de garantizar

nos corresponde al gobierno corresponde a los poderes públicos adoptar las medidas oportunas para la normalización del uso del euskera

cuando quieran el castellano y normalizar el euskera como lengua de servicio y como lengua de trabajo en los diferentes ámbitos de su competencia

le corresponde dar los pasos para seguir avanzando y posibilitar que los ciudadanos puedan utilizar la lengua

que no hay segregación es que puedan utilizar la lengua que deseen

estamos y además estamos muy gustosamente porque creemos en los derechos lingüísticos y en la convivencia lingüística estamos convencidos de que la comunicación es un instrumento clave en el sistema sanitario asegurar a los ciudadanos y ciudadanas la opción de comunicarse en su lengua

es fundamental para conseguir confianza y empatía en la relación con los médicos con las médicas con las enfermeras

y también para garantizar la calidad del servicio porque la comunicación en sanidad es garantía de servicio la confianza

en manos de un profesional es un elemento indispensable y la comunicación y la lengua lo favorecen máxime en nuestros clientes más habituales

entendemos que el plan debe determinar diferentes objetivos específicos dirigidos a garantizar e incrementar la atención bilingüe de una manera

en los derechos y niveles prefijados en el decreto sesenta y siete barra dos mil trece una ley aprobada por esta cámara entendemos que todos los servicios o unidades de osakidetza deben tener asignado su nivel de prioridad

en función de la mayor de la generalidad o cercanía de la unidad

y de la densidad de población euskaldun en la que se encuentre cada unidad en este sentido entendemos que las unidades de atención primaria o las urgencias

más especializadas y que las unidades de un centro con mayor porcentaje de pacientes euskaldunes deben tener mayor prioridad que la de otro con un porcentaje menor

las unidades con relación directa y constante con mayor número de trabajadores como los departamentos de personal las direcciones etcétera y en esa línea ha definido áreas de actuación y algunas medidas que entiende pueden favorecer la normalización

actuaciones y medidas que pretendemos implementar a través del segundo plan de euskaldunización este gobierno respeta

y los derechos correspondientes a las personas castellano parlantes que igual a usted le gustaría para ganar votos que segregáramos pero no

o antipatías que podamos tener cada uno en relación a la cuestión que nos ocupa tenemos una legislación en materia de derechos lingüísticos aprobada por esta cámara

y hacer cumplir confío en que con el mismo respeto que nosotros le mostramos a usted y a su formación política respeten los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca a los que también

sí gracias presidenta señor consejero tranquilidad relájese no se enfade sí me he leído el plan

para leerme el plan me he leído el plan he subrayado el plan lo tengo aquí delante el plan

estamos en contra reconocemos en ese plan al partido nacionalista vasco reconocemos en ese plan sus obsesiones lingüísticas conocemos lo que ustedes han hecho en el pasado

propondremos en su momento efectivamente la moción correspondiente para instar al gobierno a la retirada de ese plan aunque me quede

propondremos esa moción para retirar este plan que he leído sí pretenden segregar a la población sí

es lo que ustedes han pretendido hacer segregar a la población perjudicar a una parte de la población

beneficiar a los suyos esto es lo que han pretendido hacer prácticamente con todas las políticas y también con la política lingüística en última instancia

en las ope en las exigencias lingüísticas excesivas para acceder a un puesto de trabajo en la administración el euskera no es el problema

el problema no es el euskera ni son los euskaldunes el problema son las políticas lingüísticas aplicadas para imponer el euskera al conjunto de la población

pero no se puede olvidar que se decidió que el euskera fuera lengua oficial

una pequeña parte de la población lo conocía y por lo tanto se utilizó el hecho de que el euskera fuera lengua oficial para esas vueltas de tuerca e imponer esas medidas al conjunto de la sociedad pero el problema son las políticas lingüísticas claro que me he leído el plan se dice que otro objetivo es hacer que el euskera se convierta en la lengua de trabajo de todos aquellos servicios o unidades en el que se den las condiciones necesarias para ello por qué por qué tiene que ser así

el saludo inicial y las primeras frases serán siempre en euskera por qué tiene que ser así

en todas las unidades de recepción admisión e información por qué

a los empleados y empleadas por medio de los jefes jefas o responsables directos de cada unidad es decir la policía lingüística los trabajadores y trabajadoras de osakidetza dispensarán siempre la primera atención en euskera por qué

medio de los jefes jefas o responsables directos de cada servicio

seguimiento y evaluación la policía lingüística es fundamental que los responsables de las unidades incidan en motivar

incluso en sus relaciones internas incluso al ir a tomar un café está en el plan también obsesiones lingüísticas señor consejero

y continua con el personal se respeten los derechos lingüísticos de forma sistemática sí tiene el derecho a expresarse en euskera evidentemente usted a veces lo hace aquí lo que no se tiene es el derecho a imponer a la otra parte que hable también en euskera

pondrán especial atención y aplicaran las medidas que estimen necesarias de cara a que durante el

las reuniones de trabajo de los servicios unidades grupos de trabajo o comisiones cuya lengua de trabajo de comunicación habitual sea el euskera se realizarán siempre en esta lengua no puede mayor dirigismo ni mayor intervencionismo no puede haberlo las organizaciones de servicios pondrán en marcha proyectos o actividades dirigidos a cambiar las costumbres lingüísticas y promover el uso del euskera en las relaciones informales entre personal y empleado incluso a la hora de tomar un café presentaremos una moción porque nos parece que es claramente inconstitucional y nos parece que es una nueva vuelta de tuerca en la imposición lingüística al conjunto de la sociedad

maneiro jauna le agradezco que haya leído el plan

vuelva a leerlo sin prejuicios usted tiene alguna dificultad para ir al

bien atendido o como merece pues hay gente que la tiene y hablamos de una institución pública

oficial en la comunidad y hablamos de intentar no confrontar los derechos de nuestros trabajadores que son funcionarios públicos y los derechos de los ciudadanos que tienen derecho a

vamos a apostar por la normalización progresiva del uso del euskera vamos a apostar por el respeto

de los ciudadanos y ciudadanas vascas vamos a apostar porque el euskera y el castellano puedan ser lenguas de servicio de comunicación y de trabajo en igualdad de condiciones por ello

en otros ámbitos de la administración esto no es ninguna novedad es preciso seguir trabajando para que progresivamente en el ámbito sanitario

en la lengua que voluntariamente elijan los ciudadanos en la que voluntariamente elijan

no en la que elijan al que elija el euskera en euskera y al que elija el castellano en castellano no lo comparte usted pues bueno le parece mal que el gobierno y osakidetza sea respetuosos con los derechos lingüísticos que tiene reconocida la ciudadanía

a nosotros no le parece mal que los profesionales de la salud que lo deseen puedan visualizar su capacidad lingüística a mí no

pues a mí tampoco nunca hemos aceptado actitudes totalitarias y no las aceptamos no nos dé lecciones de convivencia democrática no nos dé lecciones de convivencia lingüística sabemos de respeto y de tolerancia estas son nuestras señas de identidad no hay en este momento con la segregación que usted dice con el primer plan de euskaldunización de osakidetza

no al revés hemos avanzado más despacio de lo que a muchos ciudadanos les hubiera gustado

que la ciudadanía y la lengua lo merecen eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

andrea lehendakaria legebiltzarkideok pues seguimos señor consejero

elaborar un registro de preferencias lingüísticas de pacientes y profesionales en osakidetza es

al idioma que hablan detrás estará el fin por el que proponen esto

errazagoa delako gaitzespena lortzea aldeko jarrerak baino estamos ante nuevas imposiciones que van contra el ritmo natural de las cosas y de la realidad en este caso lingüística y que va a ir más allá de querer impulsar el uso

en nuestra comunidad por eso también tenemos dudas incluso al encaje constitucional de estas medidas no nos vengan con la excusa de conocer la demanda existente existen suficientes encuestas sociolingüísticas y sondeos para conocer la población que habla en euskera en cada comarca y por otro lado la administración

alturas mal andaríamos por eso le preguntamos señor consejero qué pretenden recabando esa información que pertenece al ámbito de la libertad individual de cada uno de nosotros qué utilización se va a hacer de esa información son necesarias este tipo de medidas para impulsar el uso de euskera en osakidetza eso no es progresividad señor consejero

de si se aprueba este plan que ya veremos como ustedes lo plantean se dirija a mí en euskera después quizá de haber estado hablando en castellano con el compañero después

yo quiero desde mi absoluta libertad la elección de poder utilizar

o el castellano sin que me emplace a que tenga que decir cuál de ellas es de mi preferencia

ciudadanas y es lo que me gustaría hacer en osakidetza y es lo que me gustaría que se hiciera con absoluta normalidad

de que seguía lo cual se lo agradezco antes de responder a la pregunta

adopción de determinadas medidas en lo relativo al segundo plan

harago goaz paso a responderle no sin antes hacerle una observación el tiempo que dispongo para una pregunta es breve

y el detalle que el tema se merece pero entendemos que el plan debe basarse en tres principios complementarios

respeto a los derechos lingüísticos mejora de la calidad del servicio y principio de progresividad principios presentes en todo el proceso de normalización del euskera a la administración

garantizar un servicio de calidad en las dos lenguas oficiales

por otra parte entiendo que osakidetza es el ente público

y estoy convencido que la comunicación es un elemento fundamental

la buena calidad del servicio el objetivo principal del plan es garantizar la presencia y el uso del euskera como lengua de servicio está en fase de borrador y estaré encantado de que me haga las sugerencias que estime oportunas eskerrik asko

partido nacionalista vasco está priorizando sus obsesiones identitarias sus intereses partidistas a los intereses generales de los ciudadanos en un tema tan sensible como es la salud querer condicionar la demanda e impulsar este tipo de medidas que inciden en la libertad personal

empleado una cantidad ingente de recursos públicos por eso por el fracaso de sus políticas lingüísticas como pone de manifiesto en la evaluación del primero plan cuando usted mismo señor consejero dijo que solo el cincuenta y ocho por ciento de los objetivos se habían cumplido

que dedicar más recursos este año en los presupuestos a euskaldunizar

quieren pisar el acelerador en las políticas lingüísticas en contra de la demanda con todos los riesgos que eso conlleva por no hablar de las disfunciones los profesionales se valen del euskera para sacar puntos y luego eligen destinos en los que la demanda del euskera es testimonial y luego tenemos mil cuatrocientos plazas

sin cubrir estas políticas claramente generan rechazo señores nacionalistas señor lehendakari las políticas de imposición generan rechazos vemos

a como muchos por esas políticas de obligación del conocimiento del euskera estudian euskera para sacar un determinado perfil que luego ese título lo guardan

sin ánimo de polemizar me hubiera encantado que hubiera escuchado un poco

es usted bastante mejor parlamentaria que el papel que me ha hecho hoy pero bueno lo acepto el plan es absolutamente respetuoso con la legalidad vigente no tenga usted ninguna duda el plan

el plan es respetuoso con los derechos lingüísticos de la ciudadanía

el plan está inspirado en el principio de progresividad y el plan desea como no puede ser de otra manera

a impulsar la normalización lingüística y el euskera en osakidetza desde este parlamento

y la implementación de las medidas del plan podamos realizar la valoración y decir que el euskera cuenta mejor salud en lo que

es un ejemplo de planificación y anticipación a las necesidades de las personas del presente y del futuro son palabras del lehendakari que compartimos plenamente

diseñó la reordenación hospitalaria de álava una reordenación que se impulsó a pesar del pnv

un rechazo irracional carente de argumentos de base y lleno de alarmismos sin justificación aquello de la reducción de servicios sanitarios sin un solo dato que lo avalase en cambio

su posición y lo celebramos porque con sus matices con las aportaciones

esta planificación para las necesidades presentes y futuras

y contará con un amplio respaldo de esta cámara un respaldo que el consejero nos ha solicitado a los miembros de la comisión en una reunión a puerta cerrada

que también hemos reclamado esa búsqueda de consenso se produjo seis días antes de la inauguración del nuevo edificio de consultas externas y a pesar de encontrar receptividad por parte de todos los grupos

la importancia de los consensos en sanidad por el contrario según hemos visto sí ha querido contar con el portavoz municipal del pnv que encabezó

el rechazo a este proyecto por eso le preguntamos

y no a los representantes parlamentarios que son los que hacen posible este proyecto eskerrik asko

la verdad es que de haber sabido que tenía tanto interés de verdad que

vaya por delante en relación a la pregunta concreta

para invitar a la inauguración del edificio de consultas externas

como usted conoce el gobierno no tiene obligación alguna de invitar a nadie en concreto a la apertura

que pone en funcionamiento es algo que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores en el caso que nos ocupa y por cortesía que no dude que tengo con usted

la dirección del centro los jefes de servicio y supervisoras de todos los centros que componen

las direcciones del resto de organizaciones de servicios de osakidetza en araba

iba también a ese edificio el equipo del plan director corporativo de laboratorios

y del departamento de salud los arquitectos del proyecto medios de comunicación y nos parecía importante

el alcalde correspondiente del municipio en este caso el alcalde de vitoria gasteiz y además cursamos invitación a todos los portavoces de los grupos municipales a todos los portavoces de los grupos municipales además del señor lehendakari

que tiene usted conocimiento por parte del grupo municipal de su partido que no acudió nadie ni dio al respecto ninguna excusa pero llamó personalmente

señor consejero lo primero algún problema de incomunicación debe haber porque el portavoz socialista en el ayuntamiento de vitoria

y segundo no es cuestión de protagonismos ni de aparecer en una foto es una cuestión de respeto institucional este martes después de haber registrado la pregunta

su departamento nos ha invitado a participar en la inauguración del centro de salburua luego tengo que entender que usted a través de estas iniciativas ha visto que había un error y querido corregirlo este error porque ya le digo no es cuestión de protagonismos

eventos sanitarios que deben superar la tentación partidista

obviaron que esta herramienta de igualdad y cohesión social la hemos construido conjuntamente todos en esta cámara todos e hicieron un acto en el que solo estaban los responsables sanitarios de su partido eso no es conmemorar el patrimonio común de la sanidad vasca e igual que fue un consejero socialista con la colaboración imprescindible de este parlamento el que asumió y desarrollo las competencias sanitarias con un modelo que en su momento fue

fueron consejeros nacionalistas con posterioridad también con la cobertura de este parlamento quienes continuaron este proyecto

en la legislatura anterior la ordenación sanitaria de álava con un apoyo mayoritario de este parlamento

y además entonces por primera vez el pnv puso piedras en la mejora del modelo sanitario ahora buscan la senda del consenso y eso es bueno no para ustedes ni para los grupos políticos no es bueno para los ciudadanos alaveses señor consejero va a tener oportunidades a lo largo de esta legislatura de cortar cintas

lo voy a repetir y lo voy a dejar claro se dio orden de invitar

de los grupos municipales y estoy seguro de que así se hizo no obstante

de las visitas e invitaciones acaecidas en los once meses

el pasado cuatro de junio la comisión de salud y consumo visitó el instituto biocruces un proyecto calificado de prioritario en más de una intervención parlamentaria en esta cámara

ni ningún miembro de su grupo político participó en la visita el pasado diez de junio la comisión de salud y consumo fue invitada y participó en la apertura de nuevos servicios del hospital de gernika lumo

ni ningún miembro de su grupo político acudió al centro el pasado diecisiete de junio la comisión de salud y consumo visitó el hospital universitario de álava en una jornada que incluyó el hospital de santiago

y también el edificio de consultas externas y aquí creo que hay parlamentarios que estuvieron ni usted

participó en la visita no creo que el problema esté en los criterios seguidos para la organización de estas actividades y en cualquier caso repase usted

cuántas invitaciones cursó el departamento entonces de sanidad y consumo al conjunto de los miembros de la comisión de sanidad y consumo

presidenta señora consejera el programa del gobierno vasco dos mil doce dos mil dieciséis contempla entre los objetivos de medio ambiente y política territorial

la protección gestión y ordenación de los paisajes de euskadi y se promoverá la investigación difusión y puesta en valor de los paisajes singulares

no voy a entrar en antecedentes porque creo que los conoce usted muy bien y efectivamente

legislativo y normativo del gobierno vasco en impulsar un decreto de protección gestión ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la comunidad autónoma del país vasco
este decreto está ya en tramitación y podrán tener cuenta de él en breve eskerrik asko oregi andrea

señora consejera usted también conoce muy bien que cualquier actuación en protección gestión y ordenación del paisaje

directamente en los paisajes montes reforma y desarrollo agrario carreteras urbanismo administración de espacios naturales protegidos etcétera el convenio europeo del paisaje establece que es fundamental el desarrollo normativo por parte de todas las administraciones a efectos de proteger el paisaje y en particular respetando el principio de

y concretamente el convenio europeo del paisaje en el artículo cuatro habla del reparto de competencias

cinco y seis con arreglo a su propio reparto de competencias de conformidad con sus principios constitucionales y su organización administrativa

la carta europea de autonomía local sin perjuicio de las disposiciones del presente convenio cada parte armonizará

convenio con sus propias políticas señora consejera

sin hacer ninguna consulta previa a las diputaciones forales

y sabe y conoce perfectamente las alegaciones que las diputaciones

conoce perfectamente las competencias conoce el catálogo de paisajes singulares sobresalientes por ejemplo del territorio histórico de álava conoce lo que se está haciendo y a pesar de eso ustedes desarrollan una normativa

primero por un respeto institucional y competencial el parecer y la opinión de las diputaciones forales y señora consejera ese no es un buen método

ni de nada lo que hay que hacer es primero hablar con aquellas instituciones competentes y después llegar a acuerdos sobre qué se puede hacer porque

creo que debe de saber y conoce que ya hay determinadas normativas forales sectoriales por ejemplo en álava como es la norma foral de carreteras o la norma de montes tienen ya medidas que protegen por ejemplo los paisajes singulares y sobresalientes conoce el catálogo como le decía del territorio histórico de álava

es que esto se viene haciendo desde hace años y ustedes se quieren apropiar de unas competencias que son de las diputaciones por lo tanto señora consejera inicialmente primero hablar con las diputaciones y después fruto de un consenso y el diálogo y esa relación interinstitucional

señora lópez de ocariz el respeto institucional es uno de los pilares fundamentales en los que basamos nuestra labor de gobierno y desde luego mi departamento

estamos empeñados en mantener ese respeto institucional absoluto hacia las competencias de los demás y además también la colaboración en aquellas otras que sabemos

o son difíciles de definir los límites entre las competencias de unos y otros trabajamos continuamente y usted lo sabe bien articulando y coordinando tanto con las administraciones locales como con las administraciones forales en todos aquellos ámbitos de nuestra competencia para su tranquilidad le diré que efectivamente siguiendo o inspirándonos en el convenio europeo del paisaje conocido como convenio de florencia que fue aprobado por el consejo de europa en el año dos mil y al que se adhirió

estamos trabajando con esa inspiración como digo pero no queremos que el decreto que salga del gobierno sea un decreto unilateral y por eso tenemos ya en marcha trabajos de coordinación y de seguimiento con las tres diputaciones forales sí señora lópez de ocariz estamos trabajando con ellos desde el primer momento

concierne fundamentalmente al territorio a la ordenación del territorio así lo dice el convenio de florencia pero también concierne a muchas otras políticas como son las culturales las sociales las económicas etcétera estamos colaborando con las diputaciones forales como le digo

y de hecho estos días se están produciendo reuniones con la diputación foral de medio ambiente y urbanismo de la diputación foral de álava

respectivamente el proyecto de decreto que está recién terminado para iniciar esas conversaciones y también los catálogos del paisaje

la semana que viene tenemos también prevista una reunión con el diputado foral de medio ambiente de la diputación foral de gipuzkoa con el objeto de presentarle también el proyecto de decreto

para establecer los cimientos de una sólida política de paisaje a nivel de la comunidad autónoma del país vasco estos proyectos que estamos presentando a las diferentes diputaciones a los que me estoy refiriendo son tres proyectos piloto que se lanzaron en la legislatura anterior

de gran utilidad y que por supuesto vamos a aprovechar y a utilizar para avanzar en esta materia del paisaje eskerrik asko eskerrik asko